recientemente el consejo de gobierno ha aprobado un nuevo decreto de sostenibilidad energética

un decreto que según el departamento de desarrollo económico y competitividad se contextualiza en la apuesta del gobierno por las políticas de ahorro y eficiencia energética y con el que pretenden liderar acciones que puedan irse extendiendo al conjunto de edificios de la administración

qué medidas serán tomadas para mejorar la sostenibilidad energética en la administración eskerrik asko

gizartearen eta ekonomiaren ereduak kontsumo intentsiboa eskatzen dute por tanto el uso racional de la energía tiene una importancia creciente en estos momentos

al coste económico que supone para la sociedad y para todas las inversiones que debemos hacer

en cuanto a los contaminantes atmosféricos que pueden estar generándose por tanto la sostenibilidad energética un vector importante una de las principales políticas de la unión europea que a través de sus directivas establece obligaciones a los estados miembros en este tipo de actuaciones

debemos trasponer o es necesario trasponer estas normativas en este sentido

hace unos días al gobierno español por no hacerlo y en nuestro caso desde luego no queremos incurrir en esta actuación eta

este decreto se aplicará en todos los departamentos de la administración pública sus entes

es decir las entidades y entes que dependen del gobierno vasco y pretendemos reducir el consumo de energía en edificios e instalaciones y también en el parque móvil en la flota de vehículos en un veinticinco por ciento a lo largo de los próximos diez años

pretendemos llevar a cabo acciones medidas entre otros aspectos ligadas a una apuesta por el uso de energías procedentes de fuentes renovables que todos los edificios cuenten en un plazo máximo de tres años de una auditoría energética que renovemos productos que tengan alto rendimiento energético

contemos con un plan de transporte que analice costes e impactos en los traslados de personas empleadas estos son algunos de los ejemplos que pretendemos llevar a cabo además de todas las actuaciones dedicadas a lo que es rehabilitación de edificios e implantación

eficiente se trata de planes de mejora en definitiva en más de ochocientos edificios propiedad del gobierno vasco y las inversiones asociadas a este decreto se

de euros que aportarán un ahorro energético de doscientos millónes de euros esas son más previsiones que realizamos entre insisto dos mil quince y dos mil veinticinco

encaminada a garantizar la sostenibilidad futura en el consumo de energía por tanto vamos a emprender actuaciones en sostenibilidad y a la vez en

trantsitu hori burutzea se ve claramente

no se ve como lehendakari de un país soberano ni siquiera en sueños la presencia de tropas extranjeras en cualquier país es siempre un motivo de preocupación de sus responsables y más si es una presencia no deseada incluso diríamos que en términos jurídicos

en esos términos pero sí en términos de elevar una queja sobre lo que supone esta organización en el panorama político internacional sobre el rechazo que genera esta organización

bien sea para realizar un tránsito de cara a esas maniobras cuando tenemos crisis humanitarias de primer orden en europa cuando estamos viendo la incapacidad de los dirigentes de este continente para articular una respuesta digna y a la altura de las circunstancias para los cientos

que en estos momentos se plantee malgastar recursos públicos en este tipo de juegos

y denunciable y creemos que un lehendakari consciente de la sensación

a la dinámica de agresión a la dinámica de sostenimiento de unos intereses muy concretos que son los intereses

un lehendakari consciente de que la mayoría de la sociedad vasca no quiere

debería elevar su voz debería pedir que no utilicen nuestro territorio ni como lugar de entrenamiento como lugar de tránsito en estos días se está juzgando a miembros del colectivo internacionista askapena por denunciar el imperialismo de la otan eta

yankee go home ejército español iros a casa

en resumen no se han realizado maniobras militares en nuestra comunidad simplemente se produjo un desplazamiento por carretera de un convoy la ertzaintza fue informada como es preceptivo y prestó el servicio que le corresponde entrando por santurtzi podríamos hablar también de las negociaciones en las que participé

y la concepción que la izquierda abertzale tenía de las obras del superpuerto también y para qué podían ser y

atendiendo a todas las competencias que nos corresponden usted está en su derecho

un alegato contra la otan contra las guerras contra las armas contra la violencia me parece muy bien pero como usted comprenderá señor casanova

de los límites de este pleno de control al gobierno y su actuación y en todo caso a lo que es mi responsabilidad como lehendakari eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

a una personacuyo cese pidió este parlamento en febrero

que provocó el primer despido colectivo en una empresa pública después vinieron nuevas huelgas la confirmación de la descapitalización

y todo esto en medio de la inhibición del gobierno vasco la dirección no oculta su preocupación ante el difícil escenario audiovisual que debe afrontar

eficientes para revertir el deterioro paulatino que sufre en todos los ámbitos de gestión al contrario solo pretende consolidar esa gestión con un presupuesto

y que muestra muy poca confianza con los propios trabajadores del ente este escenario lógicamente no posibilita el acuerdo entre las partes implicadas tanto en los aspectos laborales

los socialistas venimos denunciando muchos aspectos de la gestión en e i te be y no nos alegramos por haber acertado cuando vaticinábamos la conflictividad que se avecinaba llevamos tiempo considerando que esta dirección no está respondiendo adecuadamente a los retos que tiene planteados en su día pedimos su dimisión como el gobierno hizo caso omiso del mandato parlamentario consideramos que es él quien debe asumir la absoluta responsabilidad de la situación en e i te be por eso
señora consejera le preguntamos qué pasos cree que debe dar la dirección de e i te be para encauzar la gestión de recursos humanos eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on señor unzalu antes de responder a su pregunta

dice usted que lo que era un problema en la radio se ha convertido en un problema laboral de todo el ente al respecto quisiera destacar que precisamente el comité de empresa de eusko irratia

cuanto menos significativo este gobierno es consciente de la dificultad existente para alcanzar acuerdos de hecho las dos principales reivindicaciones tradicionales de los comités de e i te be están limitadas por la legislación española de carácter básico desde hace años

esta es la legislatura de mayor conflictividad social en e i te be y eso creo que no lo puede dudar absolutamente nadie pero en cualquier caso los socialistas no vamos a plantear las condiciones de la negociación de cómo se tienen que llevar porque aunque nosotros apostemos por la rotundamente diálogo social ya le he dicho en mi primero intervención que eso corresponde a la dirección

es una cuestión bastante más global estamos planteando lo que es hoy en día la realidad de e i te be y uno de sus aspectos lo que es

se está reflejando en todos los ámbitos el plan estratégico se ha quedado en papel mojado después de vendido

no hay ni servicio público que concite el apoyo de la ciudadanía vasca

como se desprende de la incapacidad de afrontar los retos del mercado ni equilibrio presupuestario

del gobierno para impedir que el ente entre en la quiebra ni visión compartida con los profesionales de la casa

están cada día más lejos de los trabajadores y trabajadoras se están viviendo como le repito

señora consejera le repito nosotros hacemos responsable a su gobierno de lo que está ocurriendo en el ente de radio televisión pública vasca y no vamos a perder ocasión para exigirles que pongan orden los socialistas no estamos en contra de e i te be nosotros queremos una radio televisión pública

y que fueron ratificados posteriormente por eso vamos a exigirles también que no permitan sucesos como lo ocurrido esta misma semana cuando en una nota oficial de la casa de e i te be se llama presos políticos vascos a los que en realidad son presos de eta en una nota que anunciaba un programa cuyo contenido

deslegitimación del terrorismo póngase las pilas señora consejera propugne la paz social en e i te be

se les va de las manos y su desidia la pagamos todos los vascos y vascas muchas gracias

señor unzalu nosotros también creemos en los principios del ente pero usted se empeña en colocar el foco de atención única y exclusivamente en la dirección sin embargo también deberíamos analizar el contenido del comunicado emitido recientemente por diversos comités por ejemplo

le puedo recordar varios de los juicios ganados el relativo a la reducción salarial del cinco por ciento el ere de eusko irratia las bases de la convocatoria pública de empleo de eusko irratia

debemos recordar igualmente que la actual dirección ha defendido en los tribunales decisiones adoptadas por gobiernos y direcciones de legislaturas anteriores como la eliminación de la paga extraordinaria del año dos mil doce

del año dos mil diez por citar algunos zentzu honetan gogorarazi beharra dago denon ardura dela

señora consejera la aparición de casos de supuestos abusos sexuales a menores

ha causado una enorme alarma social alarma agravada por la inacción de su departamento

detectó cuatro supuestas víctimas de menores en centros de la ciudad en concreto el ejemplo más palmario es el que se han hecho eco los medios de comunicación hechos denunciados en dos mil trece

en el colegio luis dorado de vitoria que tras muchos esfuerzos la familia consigue trasladar de centro a su hija

que nos encontramos que justo el profesor denunciado aparece en la misma

nos puede explicar exactamente qué ha hecho su departamento en todo este tiempo cómo es posible que esto se haya podido producir qué es lo que ha fallado señora consejera

señor oyarzabal para realizar una valoración correcta de una situación más aun cuando se trata de un tema tan delicado como este

este departamento ha actuado y actúa siempre que tiene la más mínima sospecha de que algún menor puede estar viviendo una situación de riesgo para su integridad física psíquica y moral la seguridad de nuestros niños y niñas de nuestro alumnado es nuestra principal prioridad

umeen segurtasuna gure ikasleen segurtasuna horixe dugu lehentasun nagusia sería deseable que en torno a este tema tan delicado y sensible todos actuemos con el máximo respeto discreción y prudencia

tal y como se corrobora por lo manifestado esta misma semana por el fiscal superior tampoco ellos la fiscalía han visto ninguna necesidad de tomar medidas cautelares porque por lo visto no existen pruebas para ello

usted sabe perfectamente que resulta inaudito y por eso ustedes han suspendido efectivamente a ese profesor lo han sacado del centro porque resulta inaudito que el profesor denunciado incluso no habiendo pruebas porque estamos hablando

que no haya pruebas no significa que ustedes no tengan que actuar de manera preventiva mire le voy a relatar los hechos las denuncias se produjeron en el dos mil trece

en dos mil catorce relatando una serie de hechos explicándole a ustedes que

atención ni información por parte del centro no recibieron respuesta

en octubre del dos mil catorce respuesta escueta diciendo que simplemente el caso se ha archivado creo que eso es una manera fría y no adecuada de tratar a una familia cuando se está estamos ante un caso de esta gravedad

que contesta de manera escueta exactamente lo mismo

se tienen que remitir a la propia viceconsejera tratan de relatar de manera exhaustiva lo que les está pasando parece que el problema son ellos no el profesor denunciado se les niega todo tipo de atención y yo me pregunto vamos a ver

por qué luego nos tenemos que enterar en una respuesta suya a una pregunta parlamentaria en esta cámara que no existía protocolo que no existe protocolo que nuestro sistema educativo

para casos de abusos sexuales a menores en centros públicos de nuestra comunidad

por qué no se informa de las actuaciones a la familia por qué no se le mantiene informada en todo momento

de cuál es el seguimiento que se hace del profesor porque se les dice que se está vigilando al profesor pero según los padres de la menor

cómo se puede cómo puede ser que no se disponga como le decía de un protocolo

que los servicios médicos perdón quiero preguntarle qué servicios médicos puso a su disposición

en relación con el seguimiento de la familia hemos conocido por respuesta de la consejera

exhaustivo nos puede decir exactamente qué es lo que ha pasado para que se desatendiesen las alertas dadas desde el ayuntamiento de vitoria en relación con casos diversos y

creo que en mi primera intervención ya se lo he dicho no se puede hacer valoraciones con una parte de la información me parece que usted está utilizando una información sesgada también sabe que hay una interpelación que ha solicitado una comparecencia y que hay toda una serie de detalles

un grado de discreción bastante importante en un caso tan sensible y que aquí no lo está con su actitud lo está ayudando lo siento no comparto con usted una cosa es aclarar la actuación

desde el primer momento en el dos mil trece hemos actuado y no hemos dejado de actuar el mismo padre no informó al centro nosotros nos enteramos por fuera

qué es lo que ha hecho cada uno ya habrá el momento de hacer las aclaraciones pertinentes a cada punto con fechas reuniones

que esto es de ayuda a lo que estamos tratando no es de ninguna ayuda lo que está ocurriendo en estos momentos el departamento ha actuado en todo momento desde el dos mil trece protegiendo a los menores a las menores y a toda la comunidad

yo creo que es nuestro deber y no se está actuando bien en este caso en las distintas comunicaciones y reuniones que hemos mantenido tanto con el centro luis dorado inicialmente

y otros centros posteriormente como con el ayuntamiento de gasteiz a través del servicio de infancia y familia el ararteko

como estableciendo las medidas de seguimiento y vigilancia oportunas no a la niña exclusivamente a toda la comunidad nos preocupa toda la comunidad

hemos actuado en todo momento de acuerdo a la información que hemos dispuesto aunque por parte de la fiscalía de araba no haya existido una notificación oficial de la apertura de la investigación y del traslado de diligencias del juzgado

hay que tener todos los hechos y no obviar una parte y en este caso el profesor citado fue investigado y su caso cerrado que en estos momentos en los supuestos casos que están siendo investigados no tenemos indicios de que indiquen nada contra este profesor que no se encuentra imputado tal y como ha dicho el mismo ararteko que está en posesión de todos sus derechos

esa opinión coincide con toda la información que disponemos y hemos ido recabando a través de

a través de las direcciones de los centros y de inspección no obstante

ni yo ni este parlamento ni tampoco los medios de comunicación eskerrik asko

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari yo le quiero preguntar por la responsabilidad política que usted asume en lo que tiene que ver con el caso de las noticias pagadas por parte del gobierno vasco y

de determinados medios de comunicación afines al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco es decir qué responsabilidad política está dispuesto a asumir usted

le toca porque efectivamente estamos hablando de posibles delitos que son de extraordinaria gravedad estamos hablando de malversación de caudales públicos estamos hablando de fraude a las administraciones públicas y estamos hablando de prevaricación

efectivamente se ha procedido a la imputación del director de comunicación del gobierno vasco el señor

informes y expedientes al gobierno vasco el señor

ha dimitido aunque al parecer ha dimitido temporalmente y además usted tendrá que explicar exactamente en qué situación se encuentra esta persona pero en todo caso cuál es la responsabilidad política que usted asume porque esto evidentemente entendemos nosotros que el último responsable es usted es un caso que afecta a muchos departamentos del gobierno vasco pueden producirse en las próximas semanas en los próximos meses nuevas y entendemos que el último responsable es usted por lo tanto qué parte de la responsabilidad asume va a pedir perdón o va a hacer como recientemente hizo en etb decir que todo se hizo perfectamente e incluso que este gobierno ha actuado del mismo modo que actuaron otros gobiernos anteriores porque esa acusación sería ciertamente grave en todo caso cuál es la responsabilidad que usted asume en relación a esta cuestión

eskerrik asko señor maneiro quien fuera director de comunicación presentó su dimisión por el solo hecho de haber sido llamado a declarar solamente por eso mi responsabilidad política es hoy la misma que el diecisiete de diciembre de dos mil doce cuando se constituyó el actual gobierno vasco mi responsabilidad fue acudir a la diputación permanente de esta cámara el siete de julio de dos mil catorce y frente a lo que usted dice que curiosamente en la justificación lo que dice es

independientemente de cuál sea lo dice usted en la justificación de cuál sea el resultado de la investigación judicial sin duda nos encontramos ante un grave caso

todo señor maneiro usted lo dice independientemente de cuál sea el resultado de la investigación judicial mire y dice también una actuación irregular que el propio lehendakari reconoció ya en julio de dos mil catorce o sea dice que yo reconocí una actuación irregular yo

uno compromiso de transparencia por primera vez se envía a este parlamento un informe completo sobre los gastos de publicidad cada cuatro meses nunca se había hecho

supervisa además de las campañas de publicidad y esto es

además de las campañas de publicidad todos los patrocinios regulando con transparencia los criterios de distribución del gasto tercer compromiso de control por primera vez todas las propuestas de patrocinio incluyen una cláusula específica para identificar

y cuando digo por primera vez es que antes no se hacía y es a eso a lo que me refiero si usted considera que esto es irregularidades es usted el que lo está diciendo

ético la comisión del código ético señala en su informe que no aprecia motivos para considerar que nos hallamos ante un incumplimiento consciente y deliberado de la regla ética básica que impone a los cargos públicos la observancia de la ley quinto compromiso institucional

nuestra responsabilidad mi responsabilidad es cumplir con estos compromisos y no ha habido actuaciones irregulares se trata de mejorar la transparencia el seguimiento

señor lehendakari ha entregado el gobierno vasco dinero público a determinados medios de comunicación afines al partido nacionalista vasco vulnerando la ley de publicidad institucional

sí así lo piensa la mayoría de esta cámara ha pagado el gobierno vasco a determinados medios de comunicación afines al pnv a cambio de a determinados consejeros del gobierno vasco puede responder a esto efectivamente sí según usted no hay nada raro ni nada irregular

usted qué piensa hacer por cierto qué es esto de la dimisión temporal han ustedes recolocado a esta persona en otro puesto

lo puede aclarar usted o se está pretendiendo engañar a la ciudadanía esta persona efectivamente ha dimitido usted qué piensa hacer porque efectivamente el gobierno ha pagado dinero público a determinados medios de comunicación afines y esta es la realidad

que este tipo de actuaciones fueron llevabas también a cabo por gobiernos anteriores

en aquella entrevista de hace unos días está acusando a gobiernos anteriores de vulnerar

considera usted que el gobierno se ha comportado adecuadamente no va a pedir perdón todo se hizo perfectamente nosotros pensamos que todo lo contrario han actuado ustedes muy mal y fueron

la querella y de ahí la imputación y de ahí la dimisión aunque sea temporal y aunque siga cobrando dinero público esto por cierto nos lo tiene que aclarar asuma por lo tanto usted su responsabilidad pida perdón por lo menos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro yo sí que le agradecería que pidiera usted perdón cada vez que mancilla el honor de las personas de manera absolutamente infundada injustificada cuando además

y es un problema serio el que usted argumente en su justificación de que independientemente de cuál sea el resultado de la investigación judicial porque ese es el talante que usted tiene

como director por lo que ha sido llamado a declarar simplemente para no interferir en lo que es

a usted esto incluso le da igual el director de comunicación cuenta con el aval de la comisión del código ético a la que él mismo solicitó un dictamen el primer día cuenta con el aval de la reforma legal que considera que el alto cargo no debe dimitir en el momento de la investigación y sin embargo

que deja muy claro que no se ha practicado todavía ninguna diligencia de investigación y que no existe ningún indicio de criminalidad en la actuación del querellado y cuenta desde luego con mi aval como lehendakari porque ha contribuido en todo momento a cumplir los compromisos adquiridos y a informar con transparencia

tanto el departamento de empleo y políticas sociales como los departamentos de educación y de salud están desarrollando medidas

por lo que podemos afirmar que el desarrollo de esta ley se está cumpliendo correctamente eskerrik asko toña jauna urrea andrea zurea da hitza

esta ley se enmarca en una política de igualdad y por tanto vemos que no se le da el carácter que tendría que tener porque es el lehendakari urkullu el que tendría que haber salido a esta tribuna porque compete efectivamente a muchos departamentos

el desarrollo del cumplimiento de una política de igualdad de una ley que se enmarca dentro de las políticas de igualdad decía el consejero que para ellos se está desarrollando correctamente

que precisamente en comparecencias anteriores su compañero aburto hablaba de la importancia de empezar a desarrollar la ley

servicio integral a las personas transexuales que iban por detrás

tres años los colectivos las personas transexuales se sienten indignadas se sienten avergonzadas de que haya una ley que les reconoce reconoce unas garantías de derechos que se tendrían que cumplir y que a día de hoy no se están cumpliendo la

si ya se firmó ese acuerdo que se iba a firmar entre los tres departamentos para que esta medida el artículo siete de esta ley se cumpliera

de verdad le invito a que se transforme aunque sea de manera mental y se ponga en la piel

cómo tiene una ley a su favor que es vulnerada que es ninguneada el pasado veintitrés de octubre fue el día internacional de la despatologización de la transexualidad sigue habiendo en esas unidades de referencias de osakidetza con unos test

con preguntas del tipo qué le gustaría ser bailarina o bombero qué le gusta más

el tipo de patologización que sufren las personas transexuales en esta comunidad autónoma es absolutamente vergonzoso estamos

de lo que exige incluso la normativa europea de garantizar un reconocimiento jurídico del género una libre autodeterminación del género y es que ni siquiera podemos

tener un íntegro cumplimento es decir vergüenza ajena

todo el servicio integral digamos el servicio público que lleva

nos ha dicho también la falta de recursos en reiteradas ocasiones si no hay recursos no se puede llevar un trabajo integral es decir constatamos una vez más

es inactiva y que es completamente vergonzoso que una ley que lleva tres años siga sin cumplirse no podemos decir estamos llevándola a cabo estamos cumpliendo la ley y no haya palabras concretas para definir qué puntos están llevando a cabo ahora mismo señor consejero dígame

inserción laboral ochenta por ciento de tasa de desempleo entre las personas transexuales

en el abordaje dentro del sistema educativo de la atención dentro del aula de las personas con diversidad afectiva y sexual tercero el departamento que dirijo está ultimando la tramitación de los dispuestos en el artículo siete sobre la documentación administrativa

y que aprobaremos antes de finalizar este año ese es nuestro horizonte y cuarto

en el artículo nueve referente a la guía clínica quiero indicarle que el proceso para su evolución sigue su andadura y podrá terminarse durante el presente año y en este aspecto quiero indicarle que dicha guía ha adquirido una dimensión

en quinto lugar se está desarrollando campañas de sensibilización para que todos los colectivos

tengan la consideración apoyo respeto y protección que esta y otras normativas

por el balance que usted realiza del lamentable mandato de la señora iturbe como directora general de e i te be desde que fue elegida por pacto político firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi qué balance hace en relación

y no cumple objetividad informativa neutralidad ideológica respeto al pluralismo imparcialidad profesionalidad qué balance hace en relación a los conflictos sindicales y al malestar interno actualmente existentes qué tiene que decir en relación a la audiencia actual en mínimos históricos y qué tiene que ver en relación al trato que

a las víctimas del terrorismo qué es lo que tiene que decir qué balance hace del lamentable mandato de la señora iturbe durante estos últimos tres años

presidente andrea señor maneiro el pasado dos de octubre tuve ocasión de explicar la situación tan difícil y compleja en la que e i te be debe desenvolverse

una situación generada en buena parte por el duopolio existente en el mercado audiovisual español

interpretación de un medio de comunicación y utilice esa visión porque claro los datos

que depende como se den pueden llevar a conclusiones diversas argitaratu diren datuetan oinarrituta

la actividad y resultados de e i te be están sometidos a la libre voluntad de consumo que realizan los ciudadanos al seleccionar uno u otro medio y en este sentido y en este ámbito

señora consejera le he preguntado por el balance que hace usted en relación al mandato de la señora iturbe durante los últimos tres años cuál es

en relación a este mandato no ha respondido absolutamente nada qué balance hace qué le parece malo muy malo o nefasto qué es lo que le parece qué opinión tiene se siente orgullosa de cómo va e i te be de que usted en mínimos históricos

se siente orgullosa le parece que el mandato está siendo impecable o más bien malo muy malo o nefasto que es lo que yo pienso qué balance hace en relación a los principios que debería cumplir y no cumple de objetividad de profesionalidad de veracidad

el resto de la cámara y en concreto un servidor y upyd piensa que e i te be es a día de hoy una televisión nacionalista para nacionalistas cuyo máximo objetivo es vender

y proteger al gobierno eso es lo que pensamos nosotros y ese es el balance que hacemos una televisión cuyo comportamiento en relación a las víctimas del terrorismo es

que ha invitado durante los últimos tiempos a determinados tertulianos cuyo en fin pasado es nada más y nada menos que ser dirigente

este es el balance que hacemos nosotros de e i te be una televisión al servicio del nacionalismo que además está en niveles nefastos bajísimos y que además ha insultado e insulta y no protege como debería a las víctimas del terrorismo que se niega a emitir determinados documentales que tratan de contar la verdad de los hechos ocurridos o de denunciar el hecho cierto de que hay más de trescientos crímenes cometidos por eta

documentales que favorecen la visión que se quiere que se tenga la sociedad en relación a los presos

una e i te be vergonzosa que es capaz de emitir un comunicado para llamar presos políticos a los presos de eta de todo esto es de lo que tiene que hablar no analizar qué es exactamente lo que digo yo o qué he escrito yo en esa justificación yo le pregunto por el balance todo empezó mal porque todo esto comenzó con un pacto oscuro

como estamos todo esto hay que cambiarlo y evidentemente volvemos a pedir la dimisión de la señora iturbe es absolutamente

el balance de estos tres años una televisión al servicio del gobierno que además insulta a las víctimas del terrorismo y está en niveles mínimos de audiencia

se siente orgullosa el gobierno está feliz eskerrik asko maneiro jauna uriarte andrea zurea da hitza

y yo lo que he intentado es demostrar que los datos que usted ha proporcionado son erróneos eso le hace llegar a conclusiones erróneas yo simplemente he querido mostrarle que

y que los datos que le mostramos y la evolución que ha sufrido e i te be en su conjunto tanto en audiencias en disponibilidad económica situación en la que nos encontramos no son malos resulta muy fácil criticar la gestión de los demás

pero lo cierto es que teniendo en cuenta la difícil situación que se está atravesando la dirección de e i te be está manteniendo una gestión adecuada etb sigue siendo líder en los espacios informativos

las bases de la convocatoria pública de empleo de euskadi irratia han sido declaradas legales y se ha considerado la procedencia

por tanto señor maneiro aún sabiendo que siempre hay margen de mejora considero que son muchas las cosas positivas
que se han conseguido en estos años no comparto su visión eskerrik asko

accidentes con medidas de prevención garantizando formación y conocimientos con buenas condiciones de empleo luchando contra la fatiga con unos centros de trabajo adecuados con un trabajo y condiciones decentes que eviten que haya más muertos en el tajo en este caso en la mar

de esto trata lo que voy a presentar hoy en este parlamento de una conquista de derechos para los pescadores del mundo

en una actividad en la que los profesionales los pescadores sufren una altísima siniestralidad sin que apenas exista regulación alguna

de casi toda legislación existente y por ello en este convenio se establece un marco básico de las obligaciones de los armadores pero también marca obligaciones a los gobiernos para que introduzcan normas

legislaciones los sindicatos están trabajando con ahínco en cada estado y a través de sus organizaciones internacionales european transport federation o international transport federation para que

adopten el convenio ciento ochenta y ocho de la oit la adopción de este convenio es en definitiva un homenaje a los treinta millónes

que trabajan en la industria pesquera a escala mundial

del año dos mil siete la organización internacional del trabajo adoptó el convenio sobre el trabajo en la pesca dos mil siete

aproximación innovadora y global en el contexto de la globalización en el sector marítimo junto al convenio marítimo dos mil seis para los marinos ratificado entre otros países por todos los países de la unión europea

un código verdadero de trabajo o un convenio mundial para los marinos y pescadores el convenio ciento ochenta y ocho de la oit contempla todo lo que integraban los distintos convenios de la oit sobre la pesca fue concebido

tengan unas condiciones de trabajo y de vida decentes procurando establecer

aceptables para proteger a los pescadores en todos los aspectos de su trabajo en lo que constituye y sé que ustedes no tienen dudas una profesión insisto peligrosa y mayormente no regulada en un sector en el que coexisten desde pequeñas empresas dedicadas a la pesca artesanal y unas potentísimas flotas industriales

la globalización con una disparidad de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques así como de la aplicación de las normas de seguridad y control

como decía anteriormente hay más de treinta millónes de pescadores en el mundo de los que el cincuenta por ciento trabajan a tiempo completo a bordo de pesqueros para ellos y el convenio lo hace se establecen unas normas mínimas de acceso al trabajo en la pesca

aptitud sanitaria así como normas para el trabajo propiamente dicho que incluye desde el contrato de trabajo nombre del armador

cobertura médica seguridad social y un capítulo sobre seguridad y salud en el trabajo y prevención de accidentes laborales

de los tripulantes en la materia el alojamiento y sus características así como la garantía de una alimentación adecuada son también parte de este convenio en el que destacan también la dotación necesaria de los barcos y las horas de descanso

voy a citar una clave absolutamente básica para considerar las bonanzas del convenio y es la capacidad de control del mismo que se da tanto al estado del pabellón del barco pesquero como al estado del puerto donde arriben los barcos con el derecho del estado del puerto de exigir

si ha ratificado el mismo incluso a barcos de pabellón de estados que no hayan ratificado el mismo

se inscribe también en la lógica de desarrollo sostenible

la preservación de la seguridad y del medioambiente a nivel mundial

tal y como garantizan los pescadores condiciones de trabajo y de vida decentes presenta para los armadores la ventaja

al caminar hacia una competencia leal sobre las bases de reglas comunes y controladas y rechazando

a los barcos sin normas a los barcos que desde siempre todos hemos conocido como barcos piratas y que tanto daño hacen a la pesca sostenible

este convenio integra la dimensión humana en las inspecciones que hasta ahora se limitaban sobre las cuestiones técnicas regidas por la organización marítima internacional de ahí la dualidad que he comentado sobre estado de pabellón

trescientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y seis toneladas de arqueo

y una eslora media de diez coma ochenta y nueve nuestra flota la vasca solo con doscientos once buques supone un dos coma diecinueve por ciento en número de barcos pero un veinte coma noventa y tres por ciento del total del arqueo bruto

con una eslora media de veintiocho coma veintinueve metros estos datos reflejan las características específicas porque todos nuestros barcos estarían imprecados en el convenio internacional y también reflejan

la internacionalización de parte de nuestra flota los puestos de trabajo de pescadores

mientras que en euskadi contamos con mil novecientos ochenta y cinco arrantzales

apenas se ha avanzado en la ratificación del convenio ciento ochenta y ocho y creemos que desde nuestra comunidad debemos impulsar la ratificación

empezando por españa se lo debemos al mundo de la pesca al que tanto décimos defender se lo debemos a todos los pescadores que pescan en todos los océanos a los propios océanos es por ello que

esta interpelación a la consejera de desarrollo económico y competitividad ze urrats ze paso egingo ditu edo emango ditu eusko jaurlaritzak

y con el objetivo de cubrir ese vacío que sufría el mundo de la pesca como usted bien ha dicho en la

se adoptó el convenio sobre el trabajo de pesca el ciento ochenta y ocho

la número ciento noventa y nueve y estas nuevas normas internacionales fueron adoptadas por una mayoría abrumadora de votos este convenio ciento ochenta y ocho también me gustaría recordar como usted ha hecho que tiene por objeto garantizar que los pescadores gocen de condiciones de trabajo decentes

lo dice prácticamente así a bordo de los buques pesqueros en los que trabajan y en los que se hace referencia condiciones de servicio de alojamiento y comida

y fruto de ello como usted también decía hemos tenido un suceso lamentable esta misma semana de atención médica pero también de seguridad social cuando se redactó este convenio se contempló que la puesta en práctica de sus disposiciones pueda hacerse por medio de legislación

estatal de cada uno de los estados miembros pero también como consecuencia de su aplicación en convenios colectivos esta recomendación número ciento noventa y nueve que fue adoptada también en esa conferencia internacional proporciona además

pero sí me gustaría señalar que van desde la figura del propio pescador la actividad pesquera que tiene que realizar qué condiciones tiene que tener y demás pero me gustaría centrarme sobre todo en algo que usted decía al final de su interpelación y es cómo entra en vigor este convenio

establece que entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de diez estados miembros ocho de los cuales deben ser estados ribereños hayan sido registradas por la dirección general y usted mismo hacía referencia a esto

entrará en vigor para cada estado miembro insisto doce meses después de esa ratificación y a día de hoy en el ámbito internacional transcurridos ya ocho años nada menos solo cinco estados han ratificado este convenio argentina

congo marruecos y sudáfrica y además en ninguno de ellos ha entrado en vigor

en lo que respecta al estado español han trascurrido ocho años y este convenio

ni del señor rajoy pero no es que no haya sido ratificado sino que no ha habido ninguna

ninguna moción en definitiva ninguna iniciativa a este respecto no hace falta además que le recuerde que se nos impide como gobierno vasco la presencia y el tener

a pesar de ser competentes en la materia en los ámbitos de la unión europea y por supuesto de esta organización internacional de trabajo y en este escenario es donde usted señor azkue pide al gobierno vasco que impulsemos al gobierno del estado a la unión europea

desde luego es encomiable la fe que usted tiene en las capacidades de este gobierno pero desde luego conste que comparto plenamente las bondades de este texto y la necesidad de su ratificación pero es cierto que dentro de nuestras competencias entendemos que tenemos labores

antes que emprender en solitario esta cruzada a pesar insisto de que comparto con usted

además sí me gustaría recordar lo último que ha sucedido en el estado español en cortes generales relacionado con el ámbito pesquero usted recordará sin duda que el grupo nacionalista vasco en el congreso de los diputados en la tramitación de estos presupuestos últimos que han sido aprobados hizo referencia a la situación

tuvieran el reconocimiento y las condiciones de la seguridad social adecuadas como tiene el resto del sector

pero claro como tiene que volver al congreso en el congreso se vuelve a tumbar esa es la preocupación que existe en estos momentos en el estado español respecto a nuestro sector pesquero en cualquier caso de verdad

porque contará con nuestro apoyo pero no solo aquí también en el estado español una vez que sean constituidas las cortes generales después de las próximas elecciones desde luego nos tendrá a su lado para conseguir

yo le agradezco la intervención sé además seguramente

que tiene hacia los pescadores porque todos los que somos de un pueblo costero en este caso de un pueblo costero vasco tenemos un amor de verdad

pero sí me gustaría decirle algo pedir la implicación del gobierno vasco claro porque tenemos implicados trabajadores implicados

cuál es la realidad de nuestra flota o no hay pescadores que hoy estén trabajando en barcos de banderas totalmente ajenas

yo no estoy pidiendo algo que no implique evidentemente aquí a nosotros a los que representamos a los ciudadanos vascos

exigiendo una acción al gobierno vasco porque tenemos implicados y la tardanza del partido popular no la debemos tenemos que intentar desde luego

y esto es entre todos yo creo que la internacialización la globalización

yo suelo decir la cara de la izquierda en este caso y la cara de la derecha

intentan ocultar la globalización no existe

posible si va a ser una regulación de futuro y se permite esa globalización sin normas evidentemente a los que siempre se les ha permitido

pero se ponen trabas en algo que es básico si queremos una globalización imparable eso sí pero al menos justa al menos con

que no afecten al mundo del trabajo y es a los trabajadores porque son los que sufren de los que se aprovechan realmente la globalización y eso es lo que tenemos que romper y esta es una normal directamente relacionada

que están globalizadas yo insisto sabiendo

seguramente la sensibilidad existente necesitamos algo más que sensibilidad necesitamos que usted nos diga qué pasos van a dar porque hay diariamente actos con el ministerio por parte evidentemente de su consejería

tenga suficiente pescado para ser económicamente

también se contemplan estas cuestiones que insisto afectan

a los nuestros y en todos los campos existentes donde podemos actuar a nivel internacional y actuamos

especificar todos también es su obligación nuestra del gobierno vasco el plantearlo

se lo hemos planteado varias veces el tema de la ratificación

por parte de un grupo de armadores que tienen su peso hoy que están encantados de que en sus barcos haya diez indonesios solamente dos españoles que no tengan regulación y eso también seguramente pesa excesivamente en lo que llamaba la forma de ver la globalización por parte

en definitiva evidentemente seguiremos insistiendo haremos la moción oportuna y creemos de verdad que es necesario más sensibilidad pero que la sensibilidad se demuestra

pues porque la sensibilidad se demuestra andado señor azkue precisamente por eso

nuestro grupo lo hace con actos con haciendo interpelaciones mociones y todas aquellas actuaciones como le decía en el caso último

hay que seguir actuando pero depende del gobierno del estado y si por nosotros fuera lo firmaríamos mañana pero es que no tenemos representación a pesar de tener las máximas competencias y eso también

y esta es una consecuencia de problemas que se niegan en cualquier caso también le decía que

a pesar de que no se firme se puede llevar a cabo a través de convenios colectivos en los pesqueros

y a lo largo de esta legislatura nuestra relación con la secretaria general de pesca con la secretaría perdón nos hemos centrado

en tratar de poner en marcha instrumentos para desarrollar las directrices de la unión europea muy especialmente en lo que incide la flota atunera congeladora porque como usted bien dice quizás es donde más problemas tengamos empezamos por allí entre otras cosas tratando de buscar

usted también hacía referencia en su interpelación rechazando la actuación de esos trabajos sin o de esos buques que actúan prácticamente sin normas

nos encontramos que tanto a nivel estatal como a nivel foral se han publicado

en cambio no se hace ninguna referencia ni se establece ninguna ayuda fiscal en beneficios a la seguridad social aquellas en las que legisla el estado para nuestras empresas y ello por supuesto ante la perplejidad de la propia comisión europea

de cómo se puede contribuir a la competitividad si no hacíamos ningún tipo de referencia a este tipo de actuaciones a que

sobre otro tipo de beneficios en la seguridad social sin embargo lo que

inacción vamos a decir de todo este tipo de posibles actuaciones en desgravaciones fiscales en análisis que tiene que hacer el estado español y ante la inacción y

estamos insistiendo además ante el gobierno central por activa y por pasiva en que tomen nota de estas cuestiones y tengan una mayor sensibilidad pero sensibilidad solo no que actúen en este

no tenemos ningún inconveniente todo lo contrario en actuar sobre nuestros convenios colectivos continuar con el estado español hablando de la flota de atuneros congeladores incidiendo

y los principales a día de hoy a pesar de que tengamos otro tipo de actuaciones y por supuesto estaremos más que dispuestos a continuar actuando a través de las cortes generales del estado que es donde tenemos que trabajar además de las reuniones bilaterales con el ministerio a pesar de que insisto no se nos reconoce esas competencias

presidenta lehendakari miembros del gobierno señoras y señores parlamentarios bien en un pleno pasado

señor consejero de empleo y políticas sociales sobre cooperativas en este caso era un tema más general era la ley de cooperativas y que

hoy seguimos hablando de economía social en esta forma forma de ley de vivienda

cooperativas de vivienda perdón y en ese sentido hay una serie de cuestiones que valorar recientemente informaciones también sobre la cuestión sobre las cooperativas de vivienda sobre su supuesto

han tenido lugar y hemos visto que hay una necesidad

un auge importante de las cooperativas de vivienda en euskadi una implantación creciente una importancia un peso

el objeto de las cooperativas de vivienda es promover la vivienda para sus propios socios socias cooperativistas socio de una cooperativa de vivienda implica convertirse en promotor de las viviendas para posteriormente acceder a una de ellas viviendas en propiedad en alquiler por tanto los socios socias

y afrontando las pérdidas o disfrutando los posibles beneficios económicos

el abc de lo que son las cooperativas de vivienda pero ahí está la cuestión qué pasa en la actualidad qué necesidades tenemos en relación con las cooperativas

reciente del observatorio vasco de la vivienda

modelo eficaz eficiente para la promoción de viviendas de calidad también constata y dice que existe un elevado desconocimiento entre las personas que forman parte de la cooperativa entre los socios cooperativistas son cuestiones que están ahí que hay que plantear y desde luego lo dice el propio informe del observatorio vasco de vivienda hace falta dar pasos decididos para una regulación para un control para mejorar los instrumentos que

mejorar la gestión que en definitiva va a ir en consonancia con

de desarrollo de algo tan importante como es la vivienda en este país

a reglón seguido del informe del observatorio vasco de la vivienda

ponía el acento con que se han encendido las alertas las alarmas o

en el gobierno vasco en relación con esa nueva situación que ha tenido una cualitativamente algunas incidencias después de la crisis con la crisis

informe del observatorio en dos mil ocho solo uno de cada veinte viviendas

también hay que tener salvedades hay menos vpo pero en cualquier caso son elementos reseñables

donde más en bizkaia el consejo superior de cooperativas de euskadi

son sobre cooperativas de vivienda en dos mil catorce es decir hay una serie de alertas suponemos que en el gobierno vasco también en relación con la ley de cooperativas también las posibilidades que puede dar una nueva regulación con las cooperativas de vivienda

de manifiesto en esa nueva necesidad de regulación lo ha puesto de manifiesto el propio gobierno en su borrador de proyecto de ley

de cooperativas en términos generales en relación con las cooperativas de vivienda las

las tendencias del informe del informe del observatorio vasco de la vivienda son muy claras en relación con el informe que hizo sobre las cooperativas

las conclusiones una de ellas la información cuantitativa confirma la existencia de una tendencia a la mayor actividad promotora en la comunidad autónoma vasca a través de las cooperativas de vivienda

relevante se pone de relieve que esta tendencia la tendencia se asocia en buena medida con la apuesta a través de ese carácter instrumental por ese formato cooperativo por parte de empresas constructoras tradicionales algo que necesita

mejor medida la ley de cooperativas en su vigente redacción deja un amplio margen a que cualquier tipo de empresa pueda estar detrás de la construcción de una cooperativa de vivienda

entendemos asimismo las administraciones públicas a través de las condiciones y requisitos de los procesos de adjudicación han favorecido en algunos casos esa tendencia

han favorecido quizá esa situación que tenemos hoy por lo que hay que afinar y hay que regular

hecho relevante o sea vamos a entender que hay ahí terreno

por el que andar dice que las administraciones públicas podrán ayudar en la difusión y formación de los derechos y deberes de los socios

y ahí es uno de los elementos que yo me refería antes se constata la existencia de un elevado grado de desconocimiento entre los socios cooperativistas en relación al carácter societario

se habla de protocolos de actuación efectivamente y las necesidades de transparencia de información y de implicación de socios y socias cooperativistas también

vinculadas en mayor medida con los principios cooperativistas en relación

por esa indefinición o por esa falta de

concreta para bien de las cooperativas en relación con los principios cooperativistas es ligar esa fórmula tan importante de la economía social que son las cooperativas a los principios

habituales de trabajo asociado u otro tipo de cooperativas agroalimentarias etcétera forman parte de esos principios igual alguna de esas fórmulas escapa de ellos

previstas en relación con que van a seguir adelante las cooperativas de vivienda o va a volver el otro tipo de empresas

vaya a incrementarse vaya a seguir desarrollándose o menos o no pues lo que hace falta desde luego y lo que se identifica como claro es

como última conclusión vincula la cesión de uso

se reguló en la ley de vivienda recientemente aprobada por este parlamento y con el impulso cooperativo de colectivos que quieran participar activamente en

en régimen de cesión de uso como un modelo alternativo al tradicional bueno pues que conocemos en otras partes de europa son un informe claro un informe que alerta un informe que pone de manifiesto la necesidad

regulación podíamos y podemos tener un instrumento útil a través de la ley de cooperativas luego podemos seguir hablando de la cuestión pero nosotros sí que a partir de este informe y de esta puesta en manifiesto de algunas alertas en relación con una mejor

cooperativas de vivienda de una manera más efectiva y más clara pues sí que queremos saber la posición la postura del gobierno vasco y que nos diga en relación con esta cuestión puesta de manifiesto por un observatorio que también es del propio gobierno que

en relación con esta urgente necesidad normativa puesta de manifiesto por el propio gobierno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

contempla toda la información estadística que genera la viceconsejería de vivienda más el conjunto de todos aquellos estudios e informes que desarrolla sobre el sector además el observatorio es un espacio de análisis compartido de recogida de las noticias más importantes

de la realidad de la vivienda el origen de su actividad y de la planificación

diferenciados por un lado la difusión regular de las estadísticas oficiales en materia de vivienda la evaluación de las políticas públicas de vivienda y finalmente estudios e informes

e interés para el sector en cada momento puntual y esta tercera vía de trabajo del observatorio es la empleada en el caso del informe que nos ocupa que fue publicado este mes el cinco de octubre en la web del observatorio con la intención de de realizar una aproximación

promotora de vivienda protegida mediante el formato de cooperativa de vivienda la mecánica de trabajo seguida es también

porque se estableció una red de trabajo colaborativo con agentes públicos con agentes privados con expertos y activos en el mundo cooperativo

para proceder al estudio y a partir de dichos contrastes el informe procede como siempre a extraer conclusiones y proponer recomendaciones de mejora permítame señor barrio que de manera muy sucinta exponga las conclusiones más relevantes que por otro lado algunas de ellas usted

en primer lugar la ley de cooperativas deja un amplio margen a que cualquier tipo de empresa pueda estar detrás de la constitución de cooperativas de viviendas tenemos que regular este asunto

y las fuertes restricciones crediticias de las entidades financieras que se mantienen desde dos mil ocho para el sector tienen algo que ver con este fenómeno

como una herramienta para mantener parte de su actividad sin responder en todos los casos a los principios cooperativos de implicación

es cierto que hemos favorecido esta tendencia a la creciente actividad promotora porque era un signo de los tiempos a través del formato de cooperativa

ya que la proliferación de cooperativas de vivienda puede llegar a ser una exigencia y lo ha sido en ocasiones de las entidades bancarias

con el fin de reforzar garantías no siempre deseadas por los cooperativistas que lo que desean simplemente es acceder a una vivienda en segundo lugar la propia crisis inmobiliaria ha resultado un factor decisivo para disparar la promoción

a los niveles actuales en los que como usted ha señalado señor barrio una de cada tres viviendas protegidas en euskadi se promueven a través de las cooperativas de viviendas y que esto además está precisamente corroborando la afirmación que antes he hecho de las razones

impulsar a las promotoras que construyan a través de la fórmula de cooperativas de viviendas y constructoras y es que esas fuertes restricciones de crédito que están soportando muchas empresas constructoras

superando los motivos inspiradores originarios de este formato los principios cooperativos de implicación y participación de los socios

porque el nacimiento ha sido más bien por presión de las instituciones financieras que por voluntad de los socios cooperativistas hay que señalarlo y este repunte en la actividad de promoción de las cooperativas de viviendas se evidencia mediante los indicadores de actividad asociada a las consultas y a la labor de arbitraje realizada por el consejo superior de cooperativas de euskadi

cerca de la mitad de las consultas vinculadas a la prevención de conflictos en el seno del cooperativismo vasco estaban relacionadas con las cooperativas de vivienda estadística que nada tiene que ver con lo que significan las cooperativas de vivienda en el conjunto de las cooperativas

en tercer lugar este tipo de herramientas en la promoción de vivienda protegida

es cierto permitiendo el acceso a la vivienda de un número considerable de ciudadanos a un precio reducido y de calidad que es de lo que se trataba fundamentalmente con la promoción

de la vivienda finalmente y en lo que respecta a las personas cooperativistas se dan casos de desconocimiento de los compromisos reales a los que están haciendo frente con la compra de la vivienda protegida a través de cooperativa

ni siquiera han sido conscientes realmente de que estaban accediendo a la compra de una vivienda a través de ser socios de una cooperativa de vivienda

en todas sus vertientes sin conocer suficientemente esta información teniendo en cuenta estas conclusiones en el informe del observatorio vasco a la vivienda

con mucho la información y el conocimiento de los derechos y obligaciones de los cooperativistas para permitir una decisión por parte de estos al menos mejor informada

sin obviar esta propuesta debo destacar que existen actualmente

a los clientes potenciales del producto cooperativo como son

y de la viceconsejería de vivienda para este tipo de promociones siempre y cuando se promuevan obviamente a través de la condición de viviendas de protección oficial

de todos los contratos de compraventa por parte de la administración

que van desde la existencia de necesidad de vivienda el cumplimiento de su función social y la no existencia de sobre precios fundamental en nuestra actuación

y coercitivos son idénticos a los del resto de la vivienda protegida finalmente para terminar esta primera intervención tengo que resaltar la inspección regular y sistemática de todo el parque de vivienda protegida

gracias presidenta gracias señor toña señor consejero

valoración en relación con la situación hay que proteger al cooperativista como elemento fundamental y hay que desarrollar las empresas cooperativas por eso es tan importante lo que vaya a hacer ahora el gobierno vasco por eso es tan importante cómo va a proteger las cooperativas de vivienda

los cooperativistas en esa necesidad que hemos detectado de más información y de

señor toña traer la ley de cooperativas como un elemento definidor

en un anterior pleno y hay que traerla la ley antes del dos mil dieciséis desde luego

con ese fin loable de proteger a los cooperativistas

reciente ley de vivienda también en los temas menos discutidos ha puesto sobre la mesa de la función social de la política pública en materia de vivienda

de creación de vivienda y de a la vez de economía social basada en los principios cooperativistas que desde luego hay que preservar y hay que proteger por eso señor toña es tan importante traer esa ley y este de las cooperativas de vivienda

oportuno a impulsar esa exigencia esa reivindicación política de esa ley porque además es que

las cooperativas de vivienda van a ser de lo que el previsible proyecto de ley va a innovar o va a ser más avanzado lo demás muchas de las cuestiones están bien reguladas pero como dice el proyecto de ley el anteproyecto de ley que

en la ley de cooperativas prevista en esta legislatura

donde más se ha innovado en el proyecto digo

para esas necesidades que ahora se detectan es respecto a las cooperativas de vivienda

respecto de las cooperativas de vivienda manteniendo la estructura básica de diseño legislativo del cooperativismo de vivienda regulado anteriormente y compartiendo con el resto de la legislación autonómica y estatal respecto de este tipo de cooperativas se trata con la de asegurar que las decisiones básicas de la de la gestión se realicen

desde su constitución eso tiene mucho que ver con la formación con la información

los socios cooperativistas deberán en todo caso ser los protagonistas de forma que asumen el riesgo y tienen la capacidad real de decisión esas son cuestiones que hay que definir y que entendemos que el proyecto de ley que pueda venir a esta cámara lo pueda definir

potenciar y dar valor a las cooperativas de vivienda la cooperativa quisiera resolver dichos contratos se vería

al asegurarse además en todo caso la información la transparencia de todas las operaciones delegadas o no de gestión se permiten operaciones con terceros hasta un límite es decir se mantiene la obligatoriedad de la auditoría de cuentas y se introduce

en una nueva fase en un nuevo momento donde el propio borrador de proyecto habla

serán de las más beneficiadas seguramente por la claridad normativa y legislativa la concurrencia con la normativa sobre edificación y en su caso la promoción de viviendas de protección oficial

reglamentariamente lógicamente pero eso será un segundo esfuerzo a partir del primero que tiene que ser la promoción y la aprobación de la ley desde luego y en este tema bueno pues también

efectivamente las aportaciones a capital las cantidades entregadas para la edificación es decir son elementos muy importantes que vienen en lo que es un borrador

de final de año nosotros es decir esta interpelación nos va a servir para traer una moción a esta cámara que antes de este año pues venga

brevedad posible venga la ley de cooperativas porque entre otras cuestiones las cooperativas de vivienda van a ser beneficiarias
de la claridad y de la necesidad de normativas que ustedes mismos han identificado muchas gracias eskerrik asko barrio erantzuteko toña jauna zurea da hitza

a este cómo señor barrio las intenciones del departamento de empleo y políticas sociales en relación al desarrollo normativo en primer lugar de la ley tres barra dos mil quince de dieciocho de junio de la ley de vivienda recientemente aprobada regula en su disposición adicional tercer el modelo de cesión de uso o

en la promoción de vivienda libre o protegida esta

e impulso por parte del conjunto de las administraciones públicas y el propio partenariado con el tejido cooperativo y asociativo vasco

inicialmente mediante la experimentación con proyectos piloto y más tarde creando un auténtico y novedoso nicho de mercado al impulso cooperativo

participar activamente de la promoción diseño y construcción de sus viviendas en régimen de cesión de uso como modelo alternativo al tradicional complementariamente a lo expuesto desde la perspectiva ya del derecho cooperativo sustantivo

que actualmente se está tramitando es la revisión de la regulación entre las clases de cooperativas y de la cooperativa de viviendas como usted señor barrio ha señalado y en el que espero nos encontremos para enriquecerla en su trámite parlamentario en este sentido y sobre la estructura básica del diseño legislativo de la cooperativa de viviendas actualmente regulado y compartido con el resto

autonómica y estatal respecto para este tipo de cooperativas se trata con la modificación de asegurar que las decisiones básicas fundamentales en la construcción en la gestión se realicen por los propios cooperativistas

desde la constitución misma de la cooperativa y no a la fuerza esto es propiciar con una regulación más intensa la participación efectiva

tengo que advertir que la cooperativa de vivienda como toda sociedad cooperativa desarrolla una empresa

de vivienda de sus socios con la participación activa de los mismos observando o debiendo observar los principios del cooperativismo está sujeta y asume en consecuencia el riesgo empresarial inherente aunque todos conocemos casos de cooperativas de viviendas surgidas a la fuerza como consecuencia de la liquidación por crisis de la sociedad promotora y al objeto de que los compradores

sin perder las cantidades entregadas a cuenta al promotor cesado en cuanto a los elementos de control que se realizan desde el departamento de empleo y políticas sociales

que son las viviendas de protección oficial pública se viene analizando el cumplimiento de la necesidad de avalar por parte del promotor las cuantías recibidas a cuenta

recomendación que está incluida en el informe del observatorio vasco de la vivienda desde el departamento de empleo a través de la viceconsejería de vivienda y también de la de empleo

y de manera más profunda las obligaciones de las personas cooperativistas para que cada uno

somos conscientes de que es necesario mejorar la comunicación en cuanto a las obligaciones de las personas cooperativistas ya que estas personas asumen el riesgo vinculado a este proyecto empresarial en todas sus vertientes haremos un esfuerzo para que sea así también en colaboración con el consejo superior de cooperativas de euskadi quien ha colaborado en la redacción

finalmente hemos de advertir que esta labor no es solo labor de las administraciones públicas es fundamental la labor de los agentes privados implicados en la promoción de viviendas a través de cooperativas tienen que informar bien a los adquirientes de viviendas de cuáles son las obligaciones y los derechos que les afectan

que tratan de reforzar las garantías de sus créditos a veces ocultando unas prácticas que podríamos decir que no son excesivamente correctas ya que debe asegurarse que se aplican buenas prácticas

de viviendas de protección pública que afectan a personas que no

asmatuko dugu abian jarri behar ditugun neurriak personas familias que lo han dejado todo atrás y han salido en busca de un futuro más esperanzador eh bildu siempre ha tenido muy claro que las personas migrantes aportan a nuestra sociedad mucho más de lo que reciben la convivencia de diferentes culturas idiomas orígenes religiones

costumbres son aspectos que enriquecen a cualquier sociedad también a la vasca por supuesto es una aportación difícil de medir de cuantificar

lo ha hecho el último informe de ikuspegi el observatorio vasco de la inmigración

lo que muchas ya sabíamos y lo que otros sin embargo han querido ocultar cuando no tergiversar a base de medias verdades y mentiras bai

handiagoa da el informe demuestra con cifras concretas y objetivas que la aportación económica de la población inmigrante está muy por encima

educación o prestaciones sociales el informe desmonta el discurso xenófobo y falaz que algunos

tratan de extender en toda europa un mal del que por desgracia no estamos libres en euskal herria como en este mismo parlamento hemos tenido ocasión de comprobar más de una vez ikuspegi muestra cuál es la realidad

pero toda es información certera y fiable no debe llevarnos a obviar

paralela y es que en una parte sensible de esta sociedad pervive una determinada percepción acerca de las personas migrantes

contrasta con los estereotipos negativos que desafortunadamente siguen existiendo en este campo por eso esta interpelación egia da

la estigmatización de las personas migrantes nos perjudica a todos y a todas fragmenta a la sociedad

zein bi mila hamabiko krisi sakoneko sasoian y además de esta primera conclusión otras de este estudio que lo hemos

estudiado con interés quiero señalar algunas cuestiones de hecho los ingresos pasan del año dos mil ocho al dos mil doce de años de bonanza a años de crisis

cotizaciones de los inmigrantes del impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que demuestra una alta ocupación también del colectivo en el mercado laboral vasco

ni impuestos segundo en todo caso el impacto de la crisis es palpable y el saldo ha pasado

a treinta y ocho del dos mil ocho al dos mil doce en tercer lugar el impacto de la crisis económica sobre el colectivo de nacionalidad extranjera se refleja claramente en el aumento de la cuantía que reciben en el concepto de prestaciones económicas y de servicios sociales

a que es uno de los colectivos que más ha sufrido el impacto de la crisis en nuestra comunidad y que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad tal y como corroboran todos los estudios y estadísticas oficiales

los datos indican que la hipótesis extendida en nuestra sociedad de que el colectivo de nacionalidad extranjera aporta menos de lo que recibe a través del sistema de protección social no se sustenta en datos reales y tengo que asegurar a esta cámara que hemos procurado

estuviese basado en datos estrictamente rigurosos y comparativos con otros estudios que se han podido hacer por todo el mundo en quinto lugar al respecto del gasto per capita es mayor para la población autóctona con respecto a la extranjera en asuntos sociales en dos mil ocho este gasto se situaba en tres mil ciento setenta euros por persona

en el año dos mil doce estas cifras eran el margen era más reducido tres mil novecientos seis para una persona extranjera tres mil novecientos cincuenta para el total y en sexto lugar

este hecho se explica en gran parte por el relevante gasto que se hace en ciertas partidas en las que la población extranjera tiene muy poco peso

las prestaciones para la dependencia la educación superior y qué decir de las pensiones que nosotros población autóctona cobramos y que los extranjeros

finalmente y sin embargo cotizan finalmente

tenemos que destacar el claro impacto positivo de la población extranjera sobre la demografía vasca que hace que nuestra población no haya disminuido en estos últimos años

en indicadores como la natalidad como la tasa de dependencia como la tasa de envejecimiento en este sentido no podemos dejar a un lado

para el sostenimiento del estado de bienestar de estos indicadores sostenimiento del estado de bienestar fundamentalmente para la población autóctona es sostenida por la población extranjera ondorioz egindako azterlanak erakusten digu atzerritar nortasun agiriko kolektiboak

porque podemos entender que a veces puedan existir ciertas dificultades para posicionarse en contra de lo que parte de esta sociedad opina es cierto que pueda existir cierto temor o que pueda dar cierto miedo pero precisamente tenemos que trabajar para que cuando hagamos este tipo de declaraciones para que cuando pongamos en marcha este tipo de iniciativas en la sociedad se vean con absoluta normalidad

el camino que tendríamos que seguir y decíamos pedagogía porque creemos que ustedes además como gobierno saben hacerlo voy a hacerle una comparativa si ahora nos acercásemos a cualquier ciudad a cualquier pueblo a cualquier barrio y preguntásemos a cualquier vecino o vecina

quiénes se tienen que vacunar que ahora está en marcha seguramente que la mayoría

si hacemos ese mismo ejercicio con los datos que arroja el informe de ikuspegi

sería notable por eso le digo que cuando ustedes quieren hacer pedagogía quieren comunicar realmente lo consiguen porque tienen herramientas en su mano para poder hacerlo y lo que le estamos diciendo es que aproveche precisamente esas herramientas tres años de legislatura y hemos evolucionado muy poco muy poco

porque en el informe ya dicen cuáles son los grupos

los rangos de edad las personas sobre las que más tenemos que incidir porque son los que peor percepción tienen contra las personas extranjeras entonces ya nos da muchas claves para poder actuar tres años como décimos y poco hemos evolucionado sin embargo la sociedad gasteiztarra ha sido capaz de

estoy hablando de la iniciativa gora gasteiz y de pasarnos por encima a trescientos kilómetros por hora nos han pasado por encima a trescientos kilómetros por hora

y de conseguir lo que ha conseguido por qué el gobierno no por qué el gobierno

si ustedes consideran que hay que reforzar

de la dirección de política familiar y comunitaria si lo veremos en el presupuesto o no porque esto también claro también conlleva un esfuerzo presupuestario entendemos

en el fondo y en el diagnóstico estamos con ustedes y lo saben porque lo hemos demostrado en este parlamento más de una vez si estamos con ustedes en el fondo y

con ustedes a la hora de buscar soluciones y de tomar medidas en esta ocasión nos tienen a su lado nos tienen en el lado izquierdo pero nos tienen a su lado

bilbo dentro de nuestro sistema de apoyo a las personas inmigrantes y más en concreto en el foro para la integración y participación social de las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes en los trabajos que desarrolla

de participación cultura y sensibilización se promueven estos proyectos de sensibilización en la sociedad en la lucha contra la discriminación y los estereotipos contra o de las personas inmigrantes también dentro del capítulo destinado al fomento de actividades

han tenido consideración especial todos los proyectos que han trabajado en aspectos de lucha contra estereotipos y la discriminación en la población lo hemos intentado

de la red de igualdad de trato y no discriminación era berean en colaboración con doce entidades del tercer sector que trabajan en los ámbitos tanto de discriminación de la inmigración como de la diversidad afectiva sexual y del pueblo gitano

en todo aquello que posibilite la no estigmatización de las personas inmigrantes y su proceso de normalización en nuestra sociedad aukera hau

en nuestra comunidad autónoma doce mil personas se encuentran en situación lamentable de tener que aceptar empleos precarios con contratos temporales de corta duración y jornadas

con ingresos mensuales que ni siquiera cubren sus necesidades básicas razón por la cual se ven obligados a complementar sus ingresos con la renta de garantía de ingresos la quinta parte de las personas preceptoras de prestaciones sociales son personas trabajadoras que complementan sus ingresos

esta cifra se ha incrementado el cuarenta por ciento estos datos indican claramente que se está consolidando una nueva clase social la de la pobreza laboral hace un año en pleno monográfico para hacer frente al paro y a la pobreza solicitamos al gobierno vasco

elaborase un informe específico sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral e insuficiencia salarial consideramos

de los autoempleos que cubren empleos reales o de los jóvenes sin emanciparse cuya situación está encubierta por vivir con sus aitas queríamos que se pudieran adoptar medidas para paliar esta situación

de la injusta reforma laboral señor consejero consideramos que los únicos datos que conocemos son porque el grupo socialista los ha solicitado en iniciativas de control por eso ya superado con creces el plazo

le preguntamos cuándo tiene previsto el gobierno cumplir con el mandato parlamentario de presentar en esta cámara un estudio sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral
y la insuficiencia salarial eskerrik asko sarasua anderea mesedez isiltasuna

usted sabe señora sarasua que no todo está en nuestras manos pero bueno con base

podemos avanzar los siguientes datos el volumen de personas en situación de pobreza real en hogares con alguna persona ocupada ha experimentado altibajos pero se ha reducido

entre mil novecientos noventa y seis y dos mil cuatro y en ausencia de bienestar real

la mayor parte de las personas afectadas están además al margen de las situaciones de pobreza y ausencia de bienestar

matizado sin embargo por riesgos relevantes para mantener ese bienestar todo hay que decirlo por supuesto en tercer lugar

han accedido en dos mil catorce al sistema de garantía de ingresos en algún momento durante los doce meses anteriores el acceso muestra una gran estabilidad con oscilaciones entre un mínimo del tres coma uno en dos mil seis

y en cuarto lugar conviene señalar que la política de apoyo de la renta de garantía de ingresos hecha nuestra

en lo relativo a la población ocupada no se centra solo en luchar contra la pobreza sino en facilitar estímulos al empleo y en garantizar mayores niveles de bienestar a la población ocupada de ahí que un aumento del número de beneficiarios de las prestaciones

no signifique de forma inmediata y paralela un incremento de la pobreza laboral

señor consejero nos remite usted al estudio de pobreza y falta de bienestar del dos mil catorce y nos dice que no todo está en sus manos usted se ha pasado

le queda un año y le sobran tres señor consejero le recuerdo que ante nuestra insistencia se vio obligado a contestarnos con datos de su departamento

son más precarios de corta duración y de jornadas insuficientes incluso las personas que han accedido a un empleo de cierta calidad pueden necesitar volver al sistema de protección social en corto espacio de tiempo algo que se palpa en la calle y algo que nos cuentan quienes trabajan día a día con las personas en riesgo de

por eso pedimos el estudio que fue respaldado por esta cámara no porque los socialistas estemos aquí para fastidiar al gobierno ni mucho menos señor consejero al contrario

y un informe que debiera ser prioritario está sin elaborar los socialistas creemos firmemente que tenemos instrumentos en nuestras manos para decidir hacia donde esta sociedad y creemos que hay que utilizarlos en recuperar a las personas y a las familias no se pueden ni se debe condenar a esta sociedad a la pobreza estructural porque unos salarios indignos no solo condenan a las personas trabajadoras a vincularse a las ayudas sociales les deja al socaire

además condiciona la estructura del sistema público de pensiones porque incluso incrementando la actividad y el número de afiliaciones a la seguridad social estas contribuciones tan ínfimas son insuficientes para atender las pensiones actuales como está

de acudir al fondo de reserva por eso le pedimos nuevamente que hagan ese estudio y que cumpla con lo que este parlamento ha acordado

le respondo señora sarasua antes de fin de año estará el estudio

en consecuencia de lo que he dicho anteriormente

a nuestro juicio más como filtrado y selección entre personas ocupadas y no ocupadas de forma que personas que en la situación anterior a la crisis estaban ocupadas precariamente o de forma no estable

y ello hace que no haya crecido sino descendido la pobreza real de tipo laboral que se sitúa en una cifra absoluta de alrededor de cuarenta y cuatro mil personas esto quiere decir

y este nuevo fenómeno nos aboca a replantear y repensar lo que se ha venido en llamar la crisis de la ciudadanía laboral

que la dinámica del sistema productivo y en especial a través del incremento del trabajo a tiempo parcial y de la estabilización salarial

señora consejera el pasado día ocho de octubre recibimos respuesta suya a una pregunta nuestra relativa a las actuaciones llevadas a cabo por su departamento en el colegio luis dorado de vitoria ante un caso de posibles

en esta respuesta suya se afirmaba que no existe un protocolo de actuación ante supuestos abusos sexuales a menores en la escuela esto ya de por sí es cierto pero lo curioso es que el padre de una de las supuestas víctimas de uno de los supuestos abusos asegura que tanto el colegio el ararteko aseguraron que se había activado el protocolo para este tipo de casos por lo tanto esta es una de las primeras cosas que tiene usted que aclarar si existe protocolo o no existe protocolo y si es cierto que ustedes dijeron que el protocolo en marcha por otro lado aseguraba usted que se había cerrado el caso ya que se habían recogido numerosísimos testimonios y averiguaciones que concluían con la

ningún comportamiento incorrecto al profesor afectado el jueves veintidós de octubre aparecen en prensa informaciones que sostienen que la fiscalía

hubieran podido sufrir abusos por parte de este mismo profesor dejando patente

informó a su departamento de estas investigaciones en una reunión mantenida el veinte de octubre de dos mil catorce a la que asistieron

delegada de menores la delegada de educación en álava del gobierno vasco el inspector jefe de educación y el inspector igualmente fuentes del ayuntamiento de vitoria han confirmado que atendieron quejas de cuatro menores que fueron sometidos a evaluación psicológica confirmando

de los hechos denunciados y dando curso del expediente al departamento de educación se confirma de este modo que educación era conocedor de los hechos y en lugar de alejar de los menores al profesor que supuestamente cometió los abusos cerró la investigación afirmando

ni siquiera ningún comportamiento incorrecto al profesor afectado era la razón por la cual ustedes habían actuado de ese modo curiosamente es apartado hace algunos días cuando el escándalo salta a los medios de comunicación consecuencia de su respuesta escrita a esta pregunta realizada por upyd finalmente es importante destacar que tras los innumerables trámites llevados a cabo por la familia de la niña para poder trasladarla de centro resultó que que supuestamente cometió los abusos fue trasladado al mismo centro que la menor lo que como mínimo es una imprudencia temeraria en fin señora consejera usted tiene que explicar todo esto y tiene la oportunidad de hacerlo en esta interpelación no diga que lo va a explicar dentro de unos días en su comparecencia no tiene que explicar este caso hoy aquí y explicar cada una de estas preguntas que yo le he planteado es importante por lo tanto que usted explique

y explique las actuaciones llevadas a cabo habiendo estudiado el asunto a fondo y siempre teniendo en cuenta sus propias afirmaciones las afirmaciones de la delegada en álava las afirmaciones y las declaraciones del fiscal las de la ikastola a la que se trasladó a la pequeña en el mes de enero teniendo en cuenta todo eso concluimos que aquí ha habido innumerables errores se han cometido imprudencias hay contradicciones

hay mentiras planteadas y dichas por determinados representantes de este gobierno por lo tanto todo esto tiene que aclararlo usted

o no existe un protocolo al padre de una de las niñas se le dijo que se había aplicado el protocolo

ustedes dicen que no existe protocolo el hecho de que no exista un protocolo ya es grave pero es igualmente grave que el departamento mienta en relación a esta cuestión tiene que explicar las razones por las cuales ustedes señalan

de abusos cuando lo cierto es que tanto el ayuntamiento de vitoria como la propia fiscalía les informan a ustedes de ello tienen que aclararlo

ustedes dicen que no tenían conocimiento cuando efectivamente está demostrado se les informó de estos casos tiene que explicar también la falta de coordinación que se ha producido entre las distintas instituciones tiene que explicar también la tardanza en realizar

de la niña tiene que explicarlo tiene que decir por qué se tardo tanto tiene que explicar muchas cosas el que la supuesta víctima y el supuesto agresor coincidieran en la ikastola a la que se trasladó a la niña lo cual desmiente que estuviera siendo vigilado por cierto

que este profesor estaba siendo vigilado por el departamento de educación y resulta que hacen coincidir a este profesor con la niña

a la que se le traslada en el mes de enero tiene que explicarlo tiene la oportunidad de explicarlo tiene que explicar también porque dijeron ustedes que informaron a la ikastola cuando resulta que la propia ikastola

y tiene que explicar por qué el profesor fue apartado cuatrocientos tres días después de que educación conociese el caso por parte

por qué educación tardó más de un año en apartar al profesor tiene que explicarlo y tiene que explicar por qué ustedes deciden

en el momento en que este asunto sale a los medios de comunicación y no antes tienen que explicar por lo tanto por qué no protegieron a los niños y a las niñas tienen que explicarlo usted está oportunidad debería poder hacerlo tiene que responder también a la pregunta de si es cierto que el docente supuestamente investigado pasó por cuatro escuelas diferentes mientras estaba siendo investigado por abusos lo cual sería una negligencia

ya digo existen en nuestra opinión y siempre teniendo en cuenta sus propias afirmaciones afirmaciones de diferentes representantes del gobierno vasco que aquí nos encontramos ante un caso

unos casos muy graves y donde se han producido enormes errores por parte del departamento de educación entendemos salvo que usted demuestre lo contrario que se han cometido errores

contradicciones que se han cometido imprudencias y algo que creo que está perfectamente demostrado que ustedes han mentido en varias ocasiones son ya digo hechos ciertamente graves en función de la respuesta que se nos dé

consejera de educación no el asunto no es para reírse entiendo yo

este caso tiene que ser aclarado y queremos que el departamento

y diga la verdad porque se ha demostrado perfectamente durante los últimos días
un cúmulo de mentiras mantenidas por el gobierno eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

señor maneiro considero que he sido suficientemente clara en mi respuesta anterior en cualquier caso permítame que reitere y subraye las ideas principales

la seguridad de nuestros menores es la máxima prioridad del departamento de educación política lingüística y cultura en este caso ha estado garantizando en todo momento

desde que tiene la mínima sospecha de riesgo para la integridad física psíquica y moral de nuestros menores la manera de proceder ante cualquier indicio de sospecha

comienza por proteger en primer lugar al menor o a la menor supuesta víctima de abusos sexuales en segundo lugar proteger al resto de los niños y niñas y en tercer lugar preservar la presunción de inocencia de la profesora o profesor presuntamente implicado en el caso que nos ocupa se ha actuado en todo momento con legalidad profesionalidad y preservando los derechos de todos a pesar del seguimiento realizado por el departamento por los servicios sociales del ayuntamiento

el profesor no está imputado puesto que no existen pruebas de ello el propio fiscal superior lo ha corroborado esta misma semana no obstante

será la justicia la que tendrá que decidir al respecto en consecuencia reitero que no ha habido ninguna situación de riesgo para nuestros menores horregatik

informazio bilketarako prozedura egoerari hurbileko jarraipen diskretua eginez usted me pregunta por el protocolo de actuación ante este tipo de situaciones como le decía no existe un protocolo escrito que incluya las actuaciones de todos los estamentos implicados en situaciones como esta

abordar cuando antes para reforzar la necesaria coordinación interinstitucional

un plan de acción que el departamento pone en marcha cuando se detectan o se informa de estos casos los pasos que se siguen son los siguientes la primera intervención ante cualquier sospecha o denuncia es proteger a la supuesta víctima

a continuación se produce una vigilancia discreta al tiempo que se contacta con los servicios especializados de las diputaciones y ayuntamientos y al menor indicio de veracidad el departamento de educación denuncia ante la fiscalía de menores

y la experiencia adquirida durante todos estos años ha sido la principal guía a la hora de definir dicho procedimiento en todo caso este departamento considera necesario dar un paso más

se debiera incluir en dicho protocolo también al resto de instituciones implicadas a fin de garantizar la máxima eficacia debemos ser capaces de sacar algo positivo de todo esto

se contrastará con el resto de instituciones diputaciones ayuntamientos y fiscalía de menores este protocolo interinstitucional podría evitar entre otras cosas la falta de coordinación necesaria para compartir información relevante

me refiero al hecho de que la fiscalía no nos informara de la apertura de una investigación en junio de dos mil catorce esto es cuatro meses antes de que se convocara al departamento a una reunión para solicitar información dando por hecho la fiscalía que ese era el trámite de comunicación de la investigación que tenía en marcha o lo que es aún más importante

en junio de dos mil quince la información recabada por la fiscalía durante todo ese tiempo sigue siendo una incógnita para nosotros

bidez eginda según la información

a día de hoy no hay indicios ni prueba alguna de que se haya producido comportamiento incorrecto alguno por parte del profesor no se ha detectado indicio alguno ni por nuestra parte ni al parecer por parte de la fiscalía según declaraciones del señor calparsoro lo que sucede aquí es que este profesor

por una denuncia que tuvo lugar en dos mil trece una denuncia que conllevó por un lado un seguimiento observación y control por parte del departamento de educación y por otro lado la investigación de la fiscalía de menores pero todo terminó con el archivo del caso por parte del juez por falta de indicios

este departamento por precaución por responsabilidad por ofrecer la máxima garantía de seguridad hacia los menores continuó con el seguimiento y vigilancia hacia el profesor

y le aseguro que en todo este tiempo que se ha mantenido dicho seguimiento desde marzo de dos mil trece

ni mucho menos delictivo por su parte en cuanto al padre promotor de la caja en dos mil trece caso ya cerrado como ya le he dicho consideramos que la familia ha sido debidamente atendida mediante contacto telefónico continuado reuniones tanto con el centro como con el departamento

se le ofreció desde el primer momento la posibilidad de cambio de centro ofreciendo hasta siete centros disponibles sin que ninguno fuera aceptado por no tratarse del centro concreto que la familia solicitaba

la niña está matriculada en el centro que la familia deseaba y según la información trasladada por el centro la presencia de la niña transcurre dentro de la normalidad

en un caso concreto en el que el departamento lleva tiempo trabajando la misma dirección del centro

de la imposibilidad de que el profesor señalado pudiera tener nada que ver puesto que los problemas de conducta del menor habían comenzado dos cursos antes de que este profesor llegara al centro

este caso concreto fue el objeto de la reunión mantenida el veinte de octubre de dos mil catorce en la sede de la fiscalía

como el inspector jefe de álava y el inspector encargado del centro en cuestión informan que no han detectado ningún indicio que pudiera involucrar al citado profesor

en la reunión no se le comunica a la delegada que haya una investigación abierta desde hace cuatro meses

insisto ni se ha detectado ningún indicio ni ha existido riesgo para alguno de los menores